de nuevo presidenta bien la próxima semana el gobierno vasco impartirá en el escorial un curso titulado el fin de eta y la recuperación de la convivencia en el país vasco temas pendientes durante la celebración de dicho curso se emitirá una película titulada asier eta biok cuyo protagonista es un miembro de eta

aitor merino que fue amigo de la infancia del etarra asier aranguren cómo es posible tener un amigo etarra

a su amigo asier a tomar la decisión de integrarse en eta aranguren ha cumplido ocho años de prisión

ha sido nuevamente detenido por formar parte del grupo de enlace con el colectivo de presos de eta

sobre todo si extraemos algunas afirmaciones que sobre la misma se ha realizado como la realizada por el protagonista que el afecto es mucho más importante que ser miembro de eta

cómo intentar ayudar a entender que las personas que formaron parte de eta son personas con convicciones políticas que en determinadas circunstancias tuvieron que dar el paso pertenecer a la banda en cualquier caso le queremos preguntar si usted como lehendakari está de acuerdo que una parte fundamental de ese curso que un puntal de ese curso sea ese citado film en el que uno de los protagonistas es un miembro de eta condenado reincidente
y no arrepentido del dolor causado en la banda terrorista eskerrik asko llanos andrea erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora llanos conviene aclarar que este curso lo organiza la universidad complutense de madrid el formato
y el diseño del curso es el habitual en este tipo de encuentros académicos y ha sido preparado por los organizadores y su director el gobierno vasco se limita a patrocinar el curso y

los participantes y las ponencias recogen una amplia pluralidad de perspectivas en relación con la temática de paz y convivencia participan representantes institucionales magistrados expertos víctimas profesores universitarios periodistas miembros de organizaciones sociales

algunos de la relación de participantes como mejor prueba iñaki gabilondo

joaquín jiménez josé ricardo de prada josé luis de castro

josé antonio martín pallín hace usted referencia a la película asier eta biok

a usted o a mí nos puede gustar más o menos lo indudable es que aporta una historia que invita a una reflexión crítica con la violencia

también los organizadores podían haber emitido ocho apellidos vascos determinadas escenas y contenidos

invitan también a la reflexión desde un punto de vista también singular mire si usted lo que plantea es censurar una película evitar la reflexión y el debate
no cuente con el gobierno vasco eskerrik asko lehendakari jauna

mire señor lehendakari creo que su respuesta

negativamente en un aspecto creo que está usted trivializando creo que comparar que en ese curso se podía emitir ocho apellidos vascos en el mismo parámetro que se puede emitir esta película creo que es una trivialidad y creo que en un tema como en este y de

de tanta relevancia como usted no se puede permitir porque créame no tienen absolutamente

la verdad es que hay un relato que se pretende instaurar y esa pluralidad que ustedes han pedido es precisamente para ayudar a ese relato porque lo que se pretende es instaurar una imagen en la que

en escena tiene un valor importante porque lo que se pretende trasladar

por parte de la presidencia de este parlamento incluso en determinados casos es solamente la consecuencia para ustedes de un conflicto político pues bien

justificación no existe razón alguna que justifique que alguien decida integrarse en una organización terrorista

y rechazamos relatos de protagonistas condenados reincidentes y no arrepentidos por el dolor causado rechazamos relatos que están basados en la equidistancia y en la ambigüedad no podemos permitir documentos

romanticismo a la integración en eta lamentamos una vez más que se haya elegido esta versión porque hay otras películas y no precisamente ocho apellidos vascos que podrían haber sido elegidas como testigo involuntario sin libertad voces sin libertad trece entre mil o infierno vasco muchas muchas pero es evidente

porque trasladan una imagen en clara discrepancia con el mensaje que se pretende y nosotros se lo vuelvo a reiterar apostamos por un relato fiel que nos permita reconocer fácilmente

un relato que transmita a las generaciones presentes y futuras que el terrorismo no tiene ninguna justificación

en ningún caso auras románticas que traten de camuflar el dolor causado y realmente

señora llanos insisto el gobierno vasco patrocina este curso patrocina porque considera adecuado intercambiar puntos de vista en un espacio

en un contexto académico sobre las tareas pendientes que nos plantea a todos el

tareas de pasado tareas de presente tareas de futuro que confluyen en un punto central como es abrir paso a una convivencia integradora en nuestra sociedad una convivencia de futuro asentada en una visión crítica del pasado

nos lo resume todo usted en la película asier eta biok los organizadores han incluido la película asier eta biok que es ante todo

es ante todo una película reconocida cabe reconocer

a la mejor película vasca en el festival internacional de cine de san sebastián dos mil trece también fue la película ganadora del premio tenemos que ver

igualmente fue premiada en la vigésimo octava edición del festival

y el coloquio que suscite esa película como habrán suscitado otras películas en otros programas esta película suscitará el coloquio en un marco del curso

para propiciar la reflexión la película tiene un mensaje claro y directo contra la violencia directo y claro contra la violencia y no trivializo con la película de ocho apellidos vascos que creo que también la tiene

diferente la película asier eta biok a la que usted resume todo puede suscitar debate y esto es lo interesante no hay que tenerle miedo al debate

y a la censura eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

que bbk kutxa y vital hayan optado por superar los límites

es positivo que se hayan fusionado en una entidad más fuerte es positivo que ahora actualicen su realidad jurídica

en fundaciones bancarias corresponde eso sí a los órganos de gobierno de las cajas vascas adoptar los acuerdos que estimen oportunos en orden a cumplimentar esta obligación legal las cajas no pierden nada con esta decisión mantienen su personalidad mantienen su arraigo y mantienen su obra social y yo como lehendakari respeto y voy a respetar estos acuerdos de las cajas

y son positivos respeto y respaldo plenamente la decisión planteada por las cajas vascas en el fondo y en la forma a la administración pública vasca le corresponde ejercer también el protectorado tanto sobre las cajas de ahorros como sobre las fundaciones bancarias por lo tanto le corresponde velar por la legalidad de la constitución

en su caso de las fundaciones en que vayan a transformarse las cajas vascas esa es nuestra responsabilidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna isasi jauna zurea da hitza

se han negado a ello se han enrocado se han quedado solos y ahora ven que el proceso está a punto de aprobarse y pretenden pararlo y volver a empezar desde cero pretenden imponer su criterio a hacerlo

las cajas llevan tiempo trabajando y van a seguir adelante ustedes apelan al lehendakari para que manifieste su posición con respecto a las asambleas de este próximo treinta de junio pues mire me reafirmo y manifiesto en mi más escrupuloso respeto institucional a las cajas vascas mi respeto a los acuerdos adoptados

de las cajas vascas como hasta ahora ha sido siempre eskerrik asko

eta beste erantzun bat ere ikusten dugun queremos denunciar desde el grupo popular la actuación del gobierno del que usted es lehendakari de financiar medios próximos al nacionalismo y querer pasar por información lo que es mera publicidad institucional

a través de medios afines realizan propaganda y auto bombo en un claro intento de manipular a la opinión pública y de engañar a los ciudadanos hace varias semanas nuestro parlamentario iñaki oyarzabal denunciaba cómo el gobierno vasco compró espacios informativos para dar información absolutamente sesgada y partidista y lo que es más grave ir

esta práctica como hemos tenido ocasión de comprobar no ha sido un hecho aislado y se extiende a otros departamentos y estamos por lo tanto ante una estrategia determinada de comunicación

flagrante y fraudulenta estas repetidas actuaciones señor lehendakari como ya le han recordado esta mañana vulnera claramente la legalidad vigente su gobierno

está actuando en contra de la ley con entrevistas pagando informaciones y entrevistas que son claramente como decía propaganda y auto bombo

está actuando al margen de toda ética y de su propio código ético y de buen gobierno que ustedes suscribieron y que por cierto

todo lo contrario de una actuación ejemplar transparente imparcial los principios que se suponen tenían que regir la actuación de cualquier gobierno

si ahora usted me va a contestar a esta pregunta y va a rectificar y si va a seguir utilizando el dinero público para financiar ilegalmente en medios de comunicación afines

régimen de la publicidad institucional contiene dos ámbitos

de publicidad institucional que tiene unas características un contenido y un alcance y en segundo lugar existe el régimen

en este segundo aspecto es en el que se encuadra la actuación a la que usted se refería en las iniciativas a las que ha sometido a control parlamentario al gobierno en este sentido tengo que decirle señora garrido que el régimen que regula la ley de publicidad institucional en este segundo ámbito de comunicación

es más laxo y que efectivamente se puede mejorar porque estamos

señor erkoreka se ha remitido ya al parlamento una información

como corresponde las actuaciones de comunicación y publicidad a cada una de las cadenas o de los grupos de comunicación por eso en este sentido hay que diferenciar ambos regímenes y en ese régimen de comunicación y de campaña de comunicación

de fondos públicos a ningún grupo de comunicación si usted me esta diciendo que está utilizando los argumentos de la publicidad institucional que tiene un régimen

a ningún medio en las campañas institucionales de comunicación los actos institucionales de comunicación de no identificación

que es mejor proceder a una identificación tanto por parte del gobierno como por los medios de comunicación y en este sentido el gobierno humildemente acepta las criticas
aceptamos que podemos mejorar y vamos a trabajar en esa vía eskerrik asko

no doy crédito pero cómo que este gobierno acepta las críticas pero esta actuación es correcto o no es correcta

porque la propia consejera dijo que no se iba a repetir ustedes están actuando correctamente o no

están emprendiendo una huída claramente hacía delante y la prueba es que parece que

quién responde a los distintos grupos con representación en esta cámara porque cada uno

lo que considero absolutamente falta de respeto y lamentable y mire señor lehendakari por cierto lehendakari de todos los vascos se sonríe

si es que a veces se le olvida que últimamente parece que demasiado porque usted también es nuestro lehendakari

el gobierno no es su cortijo no es su cortijo particular para hacer y deshacer a su antojo

cortijo para saltarse la ley y para beneficiar y financiar a sus altavoces mediáticos por cierto con el dinero de todos el gobierno no es su cortijo para que ustedes malgasten

y hagan una política de comunicación a base de talonario y que camuflen como información lo que es publicidad ustedes están derrochando el dinero público de todos

cuando escatiman dinero por ejemplo en los planes de empleo y eso es de una gravedad importante y esta mañana lamentablemente estamos presenciando como le decía una clara huída hacía delante ustedes se están escapando y la prueba palpable es que usted no ha salido aquí a dar la cara

ustedes han engañado a los ciudadanos y lo que nos merecíamos era primero una rectificación que no la hemos visto a lo largo de esta mañana y un reconocimiento de que ustedes han actuado mal
porque la propia consejera ya dijo que se había eskerrik asko garrido andrea y por lo tanto desde el grupo amaitu zaizu denbora gatzagaetxebarria jauna zurea da

en materia de actos de comunicación institucional le reitero señora garrido analice usted en profundidad las características y lo que el gobierno anterior mejor dicho esta cámara legisló la intensidad de las características y el contenido de la comunicación institucional es distinto de la publicidad institucional se lo digo y por lo tanto en ese aspecto no hay problema de legalidad

pues sí le entiendo la cámara es plenamente soberana para regular eso le he aceptado humildemente las críticas segundo aceptamos que tenemos que mejorar en nuestra gestión en este ámbito tercer lugar aceptamos que vamos a actuar con transparencia y vamos a actuar con honestidad de manera que tanto el gobierno como cualquier medio de comunicación cuando realice actos de comunicación institucional porque los otros evidentemente tienen que ir con precisión concreta e identificación de que están financiados y que son

vamos a identificarlos y pedimos a los medios también y sobre todo también vamos a actuar con transparencia

remitir a la cámara toda la memoria de actividades de los actos de comunicación institucional y de publicidad segmentados por cada uno de los medios de comunicación y ustedes harán el análisis y la

mejorando compromiso de aceptar las críticas compromiso de mejora y compromiso de transparencia ante la cámara

y dentro de nuestra honestidad en el quehacer público porque ese es el régimen
diverso que establece la ley vigente de publicidad institucional eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

damborenea jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señor consejero esta es una
interpelación preventiva por decirlo de alguna forma más que una interpelación

la ley uno barra dos mil de veintinueve de junio

en su artículo ocho modificaba el párrafo cinco el número cinco del artículo cincuenta y siete y decía lo siguiente se considerarán financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas que a efectos de prelación de créditos se sitúen de todos los acreedores comunes es decir que son los últimos a cobrar en el caso

el pasado dieciséis de junio fagor remitió a la comisión nacional del mercado de valores

era de mil veintisiete millónes de euros y los activos doscientos setenta y dos es decir los activos no cubren el veintiséis por ciento de la deuda de estos activos también hay que decir que han desaparecido

más de quinientos millónes que supuestamente había cuando se inició el proceso concursal

que se iniciara el proceso concursal con ochocientos millónes de activos que es más del cincuenta por ciento que con menos del treinta

estar ante una quiebra o estar ante una suspensión de pagos yo le estoy dando estos datos y usted ya sabe dónde quiero llegar y por qué quiero llegar esto significa lisa y llanamente que las aportaciones subordinadas a fagor valen cero y que tal y como están las cosas

nunca nada y no van a recuperar nada de dinero y aquí es donde digamos empieza la interpelación de verdad porque como usted sabe

la inmensa mayoría de la gente que hizo esas aportaciones no eran grandes inversores

común que decidió poner sus ahorros y no estamos hablando de inversiones aquí hablamos de ahorros en este producto que teóricamente una empresa solvente perteneciente a un grupo muy solvente ponía en circulación

y esta gente evidentemente se ha quedado sin ese dinero dentro de ese grupo de gente de inversores trabajadores en paro muchos de ellos hoy amas de casa etcétera etcétera esos ahorros los pueden dar por perdidos y digo los pueden dar por perdidos porque jurídicamente los siguen teniendo porque como existe el concurso en marcha y mientras no se cierre y se liquide y se les diga ustedes lo han perdido todo teóricamente aparecen en sus cuentas en su contabilidad

que poseen esos ahorros como si valieran algo y aquí es donde viene mi interpelación con independencia de que hace un año por estas fechas este parlamento acordó que el gobierno creara un fondo ya sé que no es su ramo sino porque claro en este caso esto afecta a varios departamentos que se creara un fondo para ayudar a esta gente a financiar las acciones legales

y estamos hablando de gente que precisamente no les sobran los medios económicos

concreta al señor consejero de empleo y políticas sociales porque nuestra ley de garantía de ingresos

uno de los requisitos para poder acceder es no tener

por una cuantía máxima equivalente a cuatro veces la renta de garantía de ingresos entonces hete aquí que alguien que sus ahorros los puso en este producto financiero

literalmente este artículo de la ley de garantía de ingresos

aunque no no se me sonría porque es que yo he hablado con alguna persona que ya le ha ocurrido eso por eso le estoy haciendo esta interpelación porque como no doy crédito a que pueda ocurrir algo semejante por eso le hacemos esta interpelación ya sé que jurídicamente figuran como que puede tener cuatro mil euros invertidos o ahorrados ahí

que no los tiene ni los va a tener y por lo tanto de hecho sí se cumple sí se cumple el requisito que nosotros tenemos puesto

es si la interpretación que va a dar el departamento es que

el departamento de empleo y de políticas sociales y también el organismo lanbide conoce el tema que usted nos plantea

la preocupación por estas y por otras personas que se pueden encontrar en una situación similar a la que usted ha descrito es un tema que nos preocupa y que nos ocupa porque tal y como hemos debatido antes también detrás hay personas y familias que pasan por situaciones muchas veces de auténtico dramatismo el origen del problema es que como ocurre en muchas ocasiones

no puede imaginar no puede prever no puede tasar en un texto todos y cada uno de los extremos que la realidad nos ofrece

y ahora carecen de cualquier otro recurso no estaba expresamente

ocurre también con otros patrimonios inmobiliarios que resultan de difícil ejecución creo que solo caben dos alternativas

con lo que ello implica en trámites en plazos o bien

ha dicho realizar una interpretación que resulte adecuada a las posibilidades que la actual normativa entendemos que nos puede ofrecer

en estos momentos desde el departamento de empleo y políticas sociales somos partidarios de esta segunda opción y es lo que en estos momentos estamos haciendo en el seno de los servicios jurídicos de lanbide tal y como dieciocho barra dos mil ocho y el decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez para acceder a la renta de garantía de ingresos no se puede disponer de un patrimonio valorado

a la unidad de convivencia en ausencia total de recursos quedan al margen de esta valoración la vivienda el local de actividad profesional y en su caso también el ajuar familiar este límite de dos mil catorce se sitúa no en los cuatro mil euros permítanme la corrección sino en los treinta y uno mil seiscientos ocho euros para una unidad de convivencia unipersonal

para una unidad de convivencia de tres o más miembros el artículo cincuenta y cuatro de la ley dieciocho barra dos mil ocho establece que el patrimonio de la unidad de convivencia incluirá el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad

el decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez en su artículo veintitrés

e indica que el patrimonio de la unidad de convivencia incluirá el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad posesión

incluyendo al menos los bienes inmuebles urbanos y rústicos los títulos valores

derecho de crédito de fácil realización o dinero en efectivo

y en casos excepcionales como decíamos el ajuar familiar con respecto a los bienes inmuebles

los bienes inmuebles de difícil realización como aquellos en los que no se cuente con la totalidad de la propiedad o se tenga limitado el disfrute de tales bienes en propiedad por situaciones impuestas de usufructo o asimilables

para estos inmuebles se establecen criterios de valoración imputando el valor de la parte proporcional de la propiedad en el primer caso o descontando de la valoración el valor calculado en este caso del usufructo o

en estos casos lanbide ha definido el criterio de que un embargo de un bien inmueble por sí mismo por el hecho del embargo no necesariamente confiere al mismo la condición de inmueble de difícil realización por cuanto que el embargo no implica que el bien embargado carezca de su valor patrimonial sino que parte de su valor de ejecución servirá para satisfacer una deuda y otra parte de ser esta inferior quedaría en del propietario con respecto a bienes inmuebles y a derechos de crédito el apartado primero del artículo veinticinco del decreto señala que los títulos valores

así como el dinero en efectivo existente en depósitos bancarios a disposición de cualquiera de las personas

en términos de su valor de ejecución a continuación indica que los títulos de renta variable se valorarán por su cotización en bolsa

por su valor contable los títulos de renta fija se valorarán

es decir no existe ningún desarrollo en el decreto a diferencia de lo que sucede con los bienes inmuebles que describa en qué circunstancias podemos considerar un derecho de crédito como de difícil valoración y con qué reglas de computo se debe tratar

no con respecto a este tipo de bienes este realmente es el problema al que nos enfrentamos habría que desarrollar esta cuestión

de su literalidad podemos concluir una resolución denegatoria

son pocos los casos que se han presentado ante lanbide estas personas han presentado certificados elaborados por los administradores concursales en los que señalan las cuantías que se les adeudan y los conceptos

pendientes de liquidación depósitos los certificados mencionan que las cantidades aportadas tienen el valor de créditos ordinarios y que los intereses generados

de créditos subordinados a otros derechos de crédito de mejor tal y como usted ha señalado en función a lo establecido en la ley de cooperativas

de dichos prestamos y aportaciones han superado en los casos presentados los límites a los que hemos hecho referencia para el acceso a la renta de garantía de ingresos

somos conscientes de que dada la situación concursal en que se encuentra la cooperativa no es posible el rescate de estas aportaciones por lo menos hasta que concluya el proceso de liquidación entonces se conocerá cuál es su valor real

y su valor es incierto actualmente aunque puedo compartir con usted que dada la apelación de créditos

qué es lo que definitivamente vaya a ocurrir no somos quiénes para hacer esa apreciación por esta razón consideramos que sería conveniente tratar todas las aportaciones de socios cooperativistas a la cooperativa en liquidación

pensamos que es lo que tenemos que hacer entender que son créditos de difícil ejecución y con ello suspender su computo como patrimonio a efectos de determinación de los límites de acceso a la prestación de rgi entendemos que esta interpretación

y facilitar la ayuda a estas personas naturalmente esta consideración se mantendría mientras dura el proceso de liquidación y siempre y cuando

no desistieran de la reclamación de los derechos económicos que les pueda corresponder para hacer valer su derecho creemos que la aplicación de este criterio bueno creemos no en este caso

realizarla también con carácter retroactivo revisándose de oficio por parte de lanbide las resoluciones denegatorias que por esta causa

de las pocas que han llegado nada más muchas gracias eskerrik asko

está claro que el legislador no puede prever ni siquiera los incumplimientos de las propias leyes que se aprueban o que alguien las maneje mal y al final se produzcan hechos que más parecen delictivos

yo me quedo o me quiero quedar con que le he entendido bien al señor consejero

que va a dar lugar y va a dar pie a que aunque el señor consejero todavía estima que tienen alguna posibilidad de recuperar algún euro

siempre y cuando alguien inyecte ochocientos millónes en la quiebra para pagar a todos los

son estos los últimos en cobrar son estos yo no veo a nadie no se me ocurre que ni siquiera el gobierno vasco

de esta quiebra aparte de que no podría hacerlo legalmente y por lo tanto repito me quedo con

difícil ejecución los créditos si eso sirve para solucionar un problema que ya tienen algunas personas

y yo también sé que hoy son pocas pero a partir de octubre

y esas muchas pueden ser muchas familias que dejan de cobrar la prestación que en estos momentos están cobrando y que están en paro y se les va a acabar a partir de ese mes de octubre

según vayan pasando los meses va a afectar a mucha más gente y también nos alegramos y

que esta interpretación que nos dice el señor consejero que va a hacer se va a hacer con efecto retroactivo y a esas personas que se les ha denegado

la primera parte de su segunda intervención y quedarme con el resto

una realidad que nos afecta a la cual tenemos que darle una solución como le he explicado nos estamos ocupando de esa situación

la literalidad de la ley nos lleva a la denegación y es lo que ha ocurrido en una

con una solicitud se tramita de manera habitual y la resolución denegatoria por la aparición en el patrimonio de esas cantidades que suponen el incumplimiento de unos requisitos y porque la alternativa es la interpretación que requiere algo más que el hecho de que en una oficina en esa relación a veces bilateral con la persona que viene a solicitar la renta se pueda solventar en cualquier caso

solicitudes que tenemos en este momento digo creo que son dos con toda cautela y que incumplen por esas aportaciones

del patrimonio yo le he anticipado que soy partidario y

mi compromiso como consejero de realizar una interpretación de la norma

este tipo de supuestos y para revisar los casos de oficio y con carácter retroactivo a la fecha en la que presentaron la solicitud la primera solicitud

no obstante también me gustaría trasladar que no

la interpretación del consejero sino que en base al criterio jurídico técnico que desde los servicios jurídicos de lanbide se está trabajando en estos momentos para realizar una instrucción desde la dirección correspondiente de lanbide a todas las oficinas y que todo el mundo tenga la certeza jurídica de que está actuando correctamente en eso estamos en ese trámite estamos y esperamos solventarlo de la forma más rápida posible no quiero aventurar lo que vaya a ocurrir con el patrimonio de estas personas puedo compartir seguramente o puedo intuir de la misma manera que usted

que hagamos las cosas correctamente y que de la misma manera para el caso de que las personas afectadas finalmente de alguna manera pudieran recuperar parte de ese patrimonio realicemos las previsiones a tal efecto y

supera el límite legal previsto debiéramos aplicar un proceso de restitución de esas cantidades y en eso también estamos trabajando porque creemos que hay que trasladar

a solicitar esa prestación que la prestación es digamos provisional

se resuelva finalmente la liquidación y para ver finalmente cómo se resuelve en resumen creo sinceramente señor damborenea que el problema afortunadamente limitado en este momento a muy pocas personas está en vías de solución

muchas gracias presidenta señoras y señores parlamentarios

consejero en el parlamento recientemente representantes de la asociación

que es la organizadora de la feria del libro y disco vasco de durango comparecieron

nueve de junio ante la comisión de cultura euskera juventud y deportes del parlamento vasco y pusieron de manifiesto

los problemas y dificultades que encuentra en este momento la organización de la feria y fundamentalmente por las necesidades de financiación bien desde el nueve de junio ellos vinieron aquí hemos seguido manteniendo contactos pero también han pasado cosas desde luego la consejera nos

se hace necesaria una mayor aportación económica para poder realizar y mantener con solvencia un encuentro cultural de referencia y de calidad

de primera línea la feria se mueve en dos ámbitos el espacio de creación en euskera y la plataforma de divulgación de la cultura vasca y esta se define en euskera y también en castellano

la feria de durango en el siglo veintiuno debe de acomodarse a una actuación integral sobre la cultura vasca en un idioma u otro

sin complejos sin limitaciones por eso es bueno también

de cultura vasca también de una de sus expresiones en este caso esta feria de sus expresiones más características en relación con la

y de entender que hay que trabajar entre todos por preservar sus actuaciones

como decía antes los organizadores de la cuarenta y nueve edición

importante han alertado y alertaron que los nuevos recortes en ese momento en las ayudas que recibían de las instituciones harían insostenible este evento eso son palabras suyas y bueno después de la comparecencia pues lo que hicieron es pedir más ayudas a las instituciones para

al futuro pero al futuro inmediato a diciembre pues poder organizar en condiciones otra edición de la feria según dijeron

tras sufrir también un recorte del diez por ciento de las subvenciones lo que ellos manifestaban que redujo

de casetas de firmas editoriales discográficas y subrayaron que a falta de seis meses para la celebración de la feria

desconocían la cuantía de las ayudas que recibirían

recortes se convertiría la situación en insostenible bueno pues eso

algunas luces rojas en relación con estas cuestiones que hemos valorado antes como de importancia recordaron la importancia

y también hablaron de en relación con lo que ellos han presentado y nos han presentado

a todos su carácter estratégico por ser el mayor escaparate de esa cultura vasca además de decían ellos vertebrador de la creación y de la industria cultural bueno la verdad es que hemos

quiere supongo que a la vista de la situación porque esa comparecencia de esos contactos de algunas iniciativas parlamentarias pues quiere a la vista de esa situación creada rectificar

y bueno aquí está el planteamiento de esta interpelación ellos recordaron que el año pasado las ayudas públicas cubrieron un cuarenta y tres por ciento del presupuesto reivindicaban más apoyo institucional ellos nos dijeron

los organizadores de la feria que solicitaron al gobierno vasco que destine ciento cincuenta mil euros

el compromiso de profundizar y de avanzar en ese sentido de más apoyo económico por parte de su departamento señora uriarte vamos a ver aquí

puntuales o colaterales hay un trípode institucional fundamental

está bien claro por supuesto la diputación de bizkaia y también el que se beneficia de esa organización que es

posibilidades de participación en mayor o menor medida pero ahí está el trípode institucional fundamental y nosotros aquí en el parlamento pues es al gobierno vasco al que tenemos que requerirle y luego

el buen hacer o el hacer por lo menos de los organizadores en relación con la búsqueda del apoyo privado fundamental también para el desarrollo cultural eso es indudable bueno también en ese sentido pues los organizadores ya han hablado y

algunos planteamientos de definición estratégica en relación con la feria del libro y disco vasco de durango bueno y en ese sentido pues hablando de estas cuestiones pues

para ahora el futuro inmediato pero también un poco en relación con el futuro del compromiso del gobierno vasco en relación con la feria del libro y disco vasco de durango pues

eta guk garrantzitsua deritzogu aniztasun hori mantentzea eta sustatzea como venía diciendo hoy en día la feria de durango es el principal mercado para las novedades editoriales y discográficas

y es también un lugar de encuentro y de celebración entorno a la cultura vasca para todo tipo de públicos

por todo ello este gobierno defiende absolutamente la importancia y el papel estratégico de la azoka para la difusión

la feria es mucho más que un evento cultural es una de las principales ferias comerciales del sector de la cultura de hecho una parte importante de la financiación se obtiene

los mayores beneficiarios del impacto económico directo de la feria sin embargo

conocemos de primera mano las dificultades económicas por las que discurre la azoka en la actualidad de hecho nos hemos reunido varias veces con sus responsables y estamos en comunicación permanente esta misma semana el martes estuvimos nuevamente con ellos estamos de acuerdo en que necesitan una financiación mayor

pero necesitamos también una reflexión compartida sobre el modelo que están desarrollando y sobre los criterios para medir el impacto y el retorno tanto económico como cultural de la feria

sin opción a discutir dicho proyecto o su posible expansión sin poder participar en una reflexión profunda

sostenibilidad estoy convencida señor barrio

deben existir ciertos mecanismos de control lo cierto es que cuando se ha comenzado a hablar de una mayor financiación para el desarrollo de la feria del libro y disco vasco

recientemente hemos conocido también la proposición no de ley presentada

a incrementar la financiación otorgada a la feria de durango parecen olvidar que si realmente la feria de durango tiene una dimensión nacional resulta necesaria la implicación de otras instituciones

que a pesar de la actual situación económica la cuantía destinada a esta feria cultural lejos de sufrir reducciones o recortes ha ido aumentando en los últimos años de este modo de los setenta y tres mil ochocientos euros que se aportaron desde el gobierno vasco en el dos mil doce pasamos a noventa y tres mil ochocientos euros en dos mil trece y tenemos

hablamos de un crecimiento de un cuarenta y tres por ciento un esfuerzo considerable teniendo en cuenta los tiempos que corren pero ante la alarma generada en torno a la feria

el martes pasado nos reunimos con los representantes de la asociación gerediaga y les planteamos una serie de acuerdos lehenik eta behin jaurlaritzak bere ekarpena

una de las peculiaridades de la azoka es su gestión a través de una asociación cultural relativamente pequeña como es el caso de

sin duda alguna esta asociación ha sido capaz de llevar adelante este extraordinario evento cultural de manera elogiable durante casi medio siglo

otra peculiaridad es su doble vertiente de feria y plataforma cultural

que el gobierno vasco no es capaz de estabilidad por sí mismo el modelo de financiación de la azoka resulta necesaria la implicación

pero además y de modo muy especial resulta imprescindible definir el propio papel de las administraciones en este mapa en el que intervienen agentes y aspectos tan diferentes

estamos dispuestos a aumentar el esfuerzo económico que hacemos por ella tal y como hemos comunicado esta misma semana a la asociación gerediaga

pero sobre todo estamos dispuestos a trabajar con los responsables de la feria y el resto de las instituciones implicadas para encontrar un modelo de gestión

para que la feria tenga la estabilidad que se merece eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

uriarte por las explicaciones efectivamente acaba su intervención con una pregunta a los parlamentarios a ver si con el dinero del gobierno vasco con el que se pueda resolver los problemas bueno efectivamente eso forma parte o tiene que formar parte

de la que usted hablaba y de la que los organizadores también hablan y de la que nosotros entendemos que hay que hablar y hay que seguir hablando pero sí que es cierto que en este momento y visto

esa inyección por parte del gobierno vasco no sé si solucionará todos los problemas pero desde luego va

en principio a seguir manteniendo un nivel importante que es

en esa reflexión que usted ha dicho

y el control del dinero público yo supongo que en ese sentido

de control no lo sé en ese sentido pero los mecanismos ustedes los tienen precisamente para realizar ese control estamos hablando mucho últimamente de control de los dineros públicos en este

esa es una clave pero efectivamente eso va a la par del fomento y de la política cultural y del desarrollo

libros y discos vascos ya son muchas más las implicaciones las cuestiones de las que estamos hablando y

definición estratégica digo interesante por lo teórico hay que llenarla de contenido en cualquier caso

vivido y lo hemos visto y los que trabajamos en la comisión de cultura en este parlamento en temas culturales y estudiamos el presupuesto de su departamento el gran recorte

yo creo que hay que preparar también las cuentas del año dos mil quince y este tema tiene que tener un protagonismo esperemos que

senda de ese recorte tan dramático y ahí podamos ver la luz antes hablaba de la luz roja pues ahí podamos ver ahora alguna luz verde para

algunos temas efectivamente la feria es un punto de encuentro y eso es lo que hay que mantener

muchas empresas y nivel cultural que es lo que queremos

intensos que tiene con la fundación es lo normal y efectivamente la fundación va a tener que hacer muchas muchos deberes también y yo creo que

algunas de sus gestiones tengan que mejorar vuelvo a decir antes hablaba de la implicación privada de la

eso es básico en la cultura la implicación de los sectores efectivamente

claramente pero todo lo demás la búsqueda de la implicación de las empresas de las industrias de la cultura del arte de la comunicación eso es esencial y en ese sentido sí me gustaría a la vista de lo que usted ha hablado de la reflexión y a la vista de lo que ellos la fundación han hablado también

de reflexión porque ellos han hablado en la definición estratégica para la feria del libro y disco vasco de durango y ellos hablan de hemos iniciado recientemente un proceso de reflexión interna

y la necesidad de actualizarnos y adaptarnos a los nuevos cambios

tienen alguna clave o pueden anticipar alguna clave en esos contactos ya les han trasladado a ellos algunas necesidades que hayan detectado para la mejora

de esa feria y la consolidación y el hecho de entender que con mayúscula

de la cultura vasca en castellano y en euskera yo creo que eso es algo que hay que preservar hay que tener bien claro no sé si en ese proceso de reflexión porque hemos visto que efectivamente lo que era el libro y el disco

experimental de vanguardia la fotografía el cine a la producción televisiva a la música al periodismo etcétera o sea que yo creo que la cuestión está bien enfocada y bien encaminada pero sí que es cierto

y si las tiene ya el gobierno pues nos gustaría que nos las avanzase muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

como ya le he dicho señor barrio este gobierno apuesta claramente por el euskera por la cultura vasca

porque insisto esta feria ha sido y es una de las manifestaciones más importantes de la cultura vasca

el lugar adecuado para conocer y dar a conocer los nuevos trabajos en el ámbito cultural y además el lugar de encuentro de miles de euskaldunes y aficionados a la cultura vasca la azoka se mueve en dos ámbitos el espacio de creación del euskera y la plataforma de divulgación de la cultura vasca

este es el terreno de juego que debe ser preservado y respaldado la feria de durango del siglo veintiuno debe acomodarse a una actuación integral sobre la cultura vasca con uno

y sí pensamos que necesitamos una reflexión compartida sobre el modelo que se está desarrollando hasta ahora ha habido una evolución y como he dicho antes hasta ahora lo único que hacia el gobierno era financiar sin una participación en cómo era la evolución cómo era esa adecuación a los tiempos a los tiempos que van cambiando

tanto cultural como económicamente entonces es ahí donde tenemos que hacer una reflexión conjunta

sobre los criterios para medir el impacto tanto económico como cultural y sobre cómo tiene que ser la financiación y la participación de todas las administraciones y también si es posible

por todo ello este gobierno se siente completamente comprometido con la asociación gerediaga que ha hecho posible que la azoka de durango haya alcanzado el carácter estratégico del que goza en la actualidad tras casi cincuenta años de recorrido

resulta evidente que en la actualidad el incremento de la cuantía económica es una prioridad nosotros ya hemos dado un paso adelante

y realmente creo que ya sabrán lo que esto supone para nosotros un verdadero esfuerzo pero

en el trabajo que esta realizando la azoka en cualquier caso resulta imprescindible trabajar en permanente comunicación colaboración y coordinación para conseguir estabilizar la situación y asegurar el futuro de la feria en los próximos años no solamente con la

itotzen dituzten finantza arazoak konpontzen hace un año hace algo más de un año yo empezaba aquí mi intervención sobre este mismo asunto de las industrias culturales con estas palabras

que las están estrangulando y mucho me temo que una vez que hayan pasado otros doce o trece meses tenga que volver a decir lo mismo aquí porque usted seguirá sin haber hecho nada al respecto y sino díganme por favor que impulso está dando su departamento

vascas durante esta legislatura porque la crisis económica y la inacción de su departamento en materia de cultura están estrangulando al sector a la industria cultural vasca y es un problema muy importante tenemos

y su actividad supone cerca del cuatro por ciento del pib y el dos coma siete por ciento del empleo total

la mayoría de esas empresas además solo tiene uno o dos empleados lo que implica que es un sector constituido

una red todavía débil que es preciso proteger crear esa red sobre la que se soporta la creación y difusión de nuestra cultura es un trabajo difícil que lleva años que se puede romper para mucho tiempo si no se apoya

de subvenciones para mantener un negocio no no de actuaciones

que faciliten créditos que apoyen lo que arriesgan y lo que ya no pueden hacer por sí solos por eso es importante porque la situación ya es insostenible que apliquen medidas de choque y sin embargo

no lo ha hecho o no ha entendido que debe de hacerse unas medidas globales importantes

no aspectos particulares de detalle lo cierto además es que desde el dos mil doce los presupuestos de promoción de la cultura están estancados

lo único que han hecho en promoción de la cultura es una recomposición de las partidas aprovechan lo que destruyen para mantener a la producción cultural entubada

sin propuestas para hacer frente realmente a las necesidades de las empresas culturales

las de producir las necesidades sino con la misma importancia las de poder exhibir y explotar

sus productos culturales por eso no puedo entender que hasta ahora sí haya hecho usted algo que es relevante lo contrario de lo que se necesita

qué ha hecho usted en su lugar una vez más para reparar el daño que esa eliminación supone

porque eran seiscientos mil euros que se multiplicaban por tres en el impacto del sector total

que ha drenado ha sustraído del sistema

qué ha puesto en marcha usted a día de hoy para sustituir a kultur klub

fundamental para fomentar y facilitar el uso de los productos culturales

usted sigue hablando y no haciendo lo digo por unas recientes declaraciones en la prensa y sobre todo en periodo de crisis no aborda los problemas con ideas nuevas

por eso le hablaba del perjuicio para el sector que ha puesto eliminar el bono cultura y kultur klub porque son actuaciones importantes que incidían en los canales de distribución de la industria cultural que es donde están ahora mismo los mayores problemas

si la distribución se muere voy a ponerle un ejemplo muy concreto de todo esto nada más llegar

creo que eran siete millónes se ha perdido un millón de euros que venía de madrid para la producción en relación a las lenguas cooficiales

no hace nada para paliar una merma tan importante en la producción audiovisual y sobre todo el problema enorme de la producción en euskadi es que etb no contrata etb es el motor de lo audiovisual vasco

que ha llevado a ese sector casi a la mendicidad no se puede decir de otra manera

y que aumente vertiginosamente el paro en ese mundo le pondré un ejemplo emblemático

y ha entrado en concurso de acreedores y no hablamos de cualquier cosa hablamos de la productora que iba a hacer la película guernica treinta y tres días que iba a dirigir carlos saura con un plantel internacional como antonio banderas se hablaba

es un ejemplo hay muchas que puedo citar ante esta situación dramática del sector

en una cantidad real irrisoria eso son paños calientes es etb que tiene un problema estructural enorme y como no lo abordan no tienen dinero para lo que debería estar haciendo esa televisión pública que entre otras cosas

en el mercado vasco también y si no lo hace no sostenemos las empresas y no estaremos ayudando al mantenimiento del empleo cultural cuando es un sector que tiene además el agravante de que hay muchos profesionales desrregularizados en cuanto a las coberturas sociales

por cierto que un portavoz del pnv con argumentos sutiles

lo que aprueba este departamento como el pnv es el partido que apoya a este gobierno supongo que se aplicará usted el cuento

trece meses a iniciativa del grupo socialista y que fue apoyado por el partido popular y por el pnv precisamente para abordar la financiación de las industrias culturales porque ya nos parecía entonces un problema grave y urgente además

de incumplimiento por su gobierno y por usted concretamente de lo que decide este parlamento de acuerdo con lo que defiende ese grupo con lo que exige a voces

espero que cumpla con lo que hace trece meses se aprobó en este parlamento

qué favores le hacen aquella enmienda transaccional

de lo que aquí estamos pidiendo que el gobierno vasco

para la inversión vinculada al crecimiento empresarial dirigida

tanto a las ya consolidadas como a las de nueva creación para apoyar inversiones destinadas a ampliar líneas de negocio

activos inmateriales procesos de concentración empresarial

también para la distribución exhibición todo ello a fin de impulsar el empleo cultural por ejemplo

se hace en las fábricas de creación no se mantiene lo que había pero no se potencia algo que es vital para el sector

para garantizar por parte de estas que se abren las líneas de crédito correspondientes

el otro tipo de ayudas que había hasta que ustedes llegaron y seguía como creo que la conoce solo quiero

las ayudas financieras para combinar la ayuda a la distribución

y el mantenimiento del empleo cultural fíjese tres objetivos que podrían resumir una acción de gobierno un programa de gobierno y que aquí la oposición está dispuesta a apoyar estaba dispuesta hace trece meses cuando se aprobó esto

y el gobierno sigue sin programa propio sin actuaciones valientes que afronten

la crisis que está viviendo y sin cumplir los mandatos de este parlamento

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor reyes el pasado cinco de marzo comparecí junto con el viceconsejero de cultura joxean muñoz ante la comisión de cultura

con el objeto de presentar y explicar las actuaciones generales llevadas a cabo en materia de cultura desde el comienzo de la legislatura

actuaciones en el ámbito cultural estas semanas hemos presentado públicamente las medidas de apoyo directo al tejido cultural a través de convocatorias y las subvenciones nominativas

el programa kultura auzolanean donde el apoyo al tejido creativo y a las industrias culturales es una cuestión clave pero creo que es probable que hoy tampoco consiga convencerle

ante su pregunta creo que no hay una sola respuesta la respuesta no es simple y contundente

la crisis es fruto de una combinación de factores y las soluciones vendrán de intervenir en muchos frentes con medidas diferentes y en colaboración con diversos agentes el gobierno solo no puede ninguna institución sola puede dar respuesta a esta situación

entre diversas instituciones en un trabajo conjunto entre la administración pública y los agentes y asociaciones de ese complejo sector al que llamamos industrias culturales y lo estamos haciendo

sin pretender la verdad una verdad contundente una fórmula clara que solo hiciera falta aplicar

es también una crisis de modelos de negocio es un cuestionamiento de las políticas culturales tradicionales donde la subvención no puede ser el único medio de acción

en un marco europeo al que nos remite el plan estratégico europa creativa con una profunda mutación de los hábitos culturales

reforzar la apuesta por el tejido cultural no tenemos ninguna duda de que son los creadores y las creadoras de ese país nuestro activo más importante

insistir en el conocimiento objetivo de la situación a través del permanente análisis cuantitativo y cualitativo del estado real de nuestras industrias culturales y del contexto internacional al que se enfrentan

interdepartamentales que abarquen a la educación y cultura pero también a los diferentes aspectos del departamento de desarrollo económico y de hacienda mejorar

volveremos a hablar de kultura auzolanean y profundizar en la gobernanza compartida en una labor conjunta con las asociaciones profesionales de los diversos sectores en una colaboración permanente de la cultura hablemos de la apuesta de este gobierno por los y las creadoras de este país

lo hemos explicado públicamente que estamos haciendo un esfuerzo muy especial para aumentar en la coyuntura económica tan complicada que estamos las cuantías destinadas a la ayuda directa al tejido cultural

autónomos y pequeñas empresas productoras o promotoras ha aumentado en todos los sectores de la cultura en dos mil trece aumentó un tres por ciento con respecto al año anterior

dos mil trece al dos mil catorce otro diez por ciento en consecuencia de dos mil doce a dos mil catorce las ayudas económicas directas a los sectores culturales han crecido un trece por ciento

cerca de un millón de euros más destinados directamente a la actividad del tejido cultural pero no solo al tejido productivo

considerando que es la red de equipamientos culturales más sólida de nuestro país una herramienta fundamental para la socialización de la cultura y un factor también de dinamización de la producción editorial este año hemos destinado ciento cincuenta mil euros más a la compra del libro analógico

un esfuerzo que incide en el comportamiento de los lectores ofreciendo una alternativa viable a la piratería

el derecho al acceso a la cultura un proyecto que incide decididamente

ez da egun batean burutuko pero además de las políticas intersectoriales

interinstitucional lo hemos explicado una y otra vez hablando del proyecto kultura auzolanean

entre los veinte temas prioritarios están además del impulso al observatorio de la cultura

el fomento de hábitos culturales el análisis de las políticas fiscales en el ámbito de la cultura los nuevos modelos de negocio en el audiovisual

la digitalización y los modelos de negocio la optimización de las ayudas al teatro

que deben ser abordadas desde una posición coordinada de las instituciones en juego erakundeen artean lan egiteaz gain elkarteekin jardun behar da eragileekin

gracias presidenta bueno consejera no nos podemos entender porque hablamos de cosas distintas

explicando el problema y cómo cree que tiene que resolverlo y usted dedica siempre

a hacer una descripción histórica que puede ser un manual

al problema y luego a dar capotazos porque soluciones no tiene esa es la política de su departamento mire yo le hablo de drama en las industrias culturales de verdad

dinero y cierran de un tejido cultural que se nos cae de gente en la calle sin trabajo

y no puede acogerse a ayudas le hablo de un drama cultural

y usted me habla de estudios de coordinación de haremos le recuerdo que estamos en el ecuador de la legislatura todo lo que dice estoy dispuesto a creerlo que lo va a hacer pero si ganan

hombre un poco de seriedad me convencerá

me lo ha preguntado cuando me cuente algo concreto cuando ponga hechos sobre la mesa yo le diré me parece bien o mal escasos o no o tendrían que haber sido de otra forma le daré mi o le apoyaré sinceramente

me parece que ya está en fin dice usted que la solución está entre distintos departamentos de gobierno vale bien qué están haciendo cómo es posible que salga aquí a responder a una interpelación directa sobre cosas concretas que le he preguntado varias veces debate presupuestario hace un año y no es capaz de decirme de salir de ese enroque de que lo están pensando les importa mucho lo van a hacer distintos departamentos del gobierno magnífico qué están haciendo haciendo

están estudiando y se están coordinando cuánto dinero han puesto dice usted que los creadores son la

entonces estos creadores no entienden nada tiene que comunicarse más con ellos

una segunda reunión este mes hubo más de ciento veinte

y asistieron ante la pasividad de su departamento y trabajaron un plan de medidas urgentes para sacar al sector de la crisis unos señores que no tienen oficina que son de la cultura que lo están pasando mal eso no es auzolanean eso no es un papel es gente que en sus carnes está sufriendo el problema

de todos los colores políticos para proponerle ellos a usted medidas bueno a ver si sale algo de ahí por lo menos dice usted que han apostado por la red de bibliotecas públicas sí

en la red esta de bibliotecas públicas la primera apuesta es que esté santurtzi es que esté bilbao

pero eso y si no pues mejor uno deja y es verdad es difícil

pero hombre no es un ejemplo de que esté funcionando bien

se definirán líneas de financiación pero cómo que se definirán nada más llegar las que había para el audiovisual aquí se aprobó que tenía que hacer una

y ahora me anuncia que va a hacer una elimina no cumple el mandato parlamentario y va a hacer una cuándo en qué consiste con qué dinero dirigida a quién

que usted conjugaba sobre todo el futuro que desconocía el pretérito perfecto yo he hecho y que conjuga muy mal el presente yo hago

en traer alguna cosa concreta aquí aunque sea una para que podamos

en subvenciones es lo que ha quitado del bono cultura de kulturclub

a mal porque ha quitado ha drenado dinero del sistema un dinero que ha quitado de iniciativas que funcionaban
no ha hecho otra cosa eskerrik asko reyes jauna uriarte andrea zurea da hitza

debemos defender la igualdad de oportunidades en el acceso de crédito de los sectores industriales incluido el de la industria cultural por ello nuestra labor consiste en asegurarnos que los demás departamentos

para ello trabajamos en estrecha colaboración con el departamento de hacienda y con elkargi

que valora las peticiones de financiación de las convocatorias de hacienda porque consideramos que resulta necesario al hilo de lo establecido en el informe de la comisión anteriormente mencionado que ofrezcan interlocutores específicos para las empresas culturales y creativas en cada oficina territorial cosa que ya ha ocurrido

y para ofrecer servicios y conocimiento adaptados a nuestro sector así mismo le diré que en octubre del pasado año conseguimos que la entidad avalista especializada en el sector audiovisual sgr y la entidad avalista

firmaran un convenio que permite a las empresas vascas de la industria audiovisual ver incrementado el importe límite

esto significa que las más de ciento treinta productoras vascas puedan financiar sus proyectos audiovisuales en mejores condiciones

y en euskera y sin duda alguna un balón de oxigeno para la industria audiovisual en euskadi

y ocupa casi a mil empleados como puede ver este gobierno está llevando acabo una labor importante de acompañamiento e intermediación una labor que resulta esencial en el acceso a nuestras industrias culturales a la necesaria financiación y sobre todo

y también en relación en esta relación interdepartamental se está llevando acabo un análisis de las políticas fiscales en el ámbito de la cultura donde las participaciones de las haciendas forales es imprescindible así mismo estamos estudiando las nuevas tecnologías y formatos audiovisual y nuevos modelos de negocio como la elaboración de un plan de actuación para la distribución y difusión del cine en euskera

algunas ya vamos dando pasos igual no todos que a usted le gustara pero bueno el cambio que supone en la situación económica en la que nos encontramos

se hace muchísima falta la colaboración entre distintas instituciones distintos departamentos y estamos trabajando en ello

sinestezina onartezina a pesar de las diferentes declaraciones realizadas por el gobierno vasco mostrando

no recoge el sentir de toda la comunidad educativa y aplica parte de esa ley lehenengo erreakzioak ezagutu ditugu hortxe dago eigerena

seriotasunetik bideratuz debe usted entender que este gobierno debe preservar el sistema educativo vasco por un lado a través de orientaciones a los centros escolares solicitadas por los propios centros relativas a la organización del próximo curso escolar a fin de no dejar el sistema educativo vasco al albur de los acontecimiento

emandako erantzunagatik baina no me lo creo es que no me lo creo zuk esan didazu hemen

están aplicando ustedes la lomce eta galdetu dizut lehenengo partean

no nos podemos permitir poner en riesgo el futuro académico del alumnado llevando a una suerte de

por ello precisamente se han facilitado las necesarias orientaciones a los centros

no nos rendimos se trata de actuar de manera inteligente para preservar la calidad del sistema educativo vasco sin poner en peligro a la comunidad educativa hau da gure erantzuna hau da gure helburua

señora consejera finalmente va a restaurar usted el programa de becas de excelencia cuándo cómo

tal y como se comunicó a este parlamento en el mes de enero atendiendo a la pnl aprobada

algunas mejoras y recogerá de forma explícita el concepto de excelencia en combinación con el rendimiento y el aprovechamiento académico para ello el departamento de educación política lingüística y cultura ha introducido en la convocatoria de beca general del curso dos mil catorce dos mil quince un tercer anexo cuyo título es el siguiente becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento para el curso académico dos mil catorce dos mil quince

que se han de cumplir para ser acreedor de las ayudas con la que se premia al estudiante becario general

señora consejera cuando usted asumió la responsabilidad en el departamento de educación se encontró con un programa en funcionamiento el programa de becas de excelencia

ciento ochenta alumnos enrolados ciento cincuenta en las universidades vascas treinta en universidades del resto del estado

usted pudo haber tomado varias opciones con respecto a ese programa de becas de excelencia un programa que

modesto no llegaba a uno millón de euros había sin embargo una línea de incentivación del talento muy importante del talento propio

usted pudo tomar varias opciones opción a seguir con el programa por su alta valoración no lo hizo opción b no seguir con el programa cerrar el programa y comunicarlo tampoco lo hizo

decir que seguía con el programa para luego afirmar que no seguía con el programa

escuchar el debate del parlamento con todas estas opciones señora usted finalmente ha decidido en la indecisión por la confusión de tal manera que

en ese programa y sus familias y déjeme decirle que hay familias que no hubieran llegado con sus hijos a la universidad y mucho menos a una universidad externa a euskadi sin ese programa han venido han ido han preguntado

a ustedes a mí no han obtenido respuestas por parte del gobierno

orientarlo a través de rendimiento económico de doscientos euros va a generar finalmente un nuevo programa de becas de excelencia

en todo su derecho pero mire usted solamente le voy a decir dos cosas

y el programa de becas de excelencia es del gobierno vasco no de su antecesora y usted tiene una obligación primero para preservar efectivamente la buena imagen del gobierno vasco pero sobre todo con los administrados con esos jóvenes que estaban enrolados en ese programa

sus opciones en función de las expectativas que había abierto ese programa por lo tanto usted tiene toda la legitimidad y toda la legalidad para abrir su propio programa seguramente no será el modelo que nosotros por lo que voy oyendo

pero usted tiene responsabilidades que cumplir

usted tiene que cerrarlo escalonadamente como generalmente suele hacerse con los programas cuando se cambian por eso señora hable con las familias diga claramente a cada uno de los alumnos enrolados en ese programa con una carta

infórmeles de lo que va a ser su futuro y a continuación cumpla con sus responsabilidades económicas finalmente usted señora

por menos de uno ese programa no se va a resentir cumpla con sus obligaciones señora consejera

el fomento de la calidad y de la excelencia en la enseñanza y en la investigación es uno de los principios informadores del sistema universitario vasco

culturales y económicos de la sociedad vasca y de las personas que habitan en ella también es a la situación en la que nos encontramos por ello tal y como he mencionado en mi anterior intervención este gobierno realiza un análisis de becas y ayudas concedidas con el departamento

y ha buscado el mejor modo de impulsar y valorar el rendimiento académico entre los estudiantes de beca general hablaremos con las familias por supuesto pero tenemos claro que como consecuencia de dicho análisis se ha decidido impulsar los conceptos de rendimiento académico y aprovechamiento académico

beneficiario de la beca general todo ello con el objetivo de premiar el esfuerzo de las y los estudiantes e incentivar una mejora en su rendimiento académico honela

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi la dirección general de e i te be con el aval expreso del gobierno está empeñada en seguir adelante con la convocatoria pública de empleo

porque cuenta con la mayoría política la que le presta euskal herria bildu empleo público lo va a hacer en contra de la mayoría sindical y con el rechazo expreso del conjunto de la plantilla manifestada en una serie de movilizaciones que culminaron en una huelga inédita en eusko irratia y lo va a hacer aun cuando en la propia convocatoria admiten que ni siquiera saben el destino de quienes aprueben

las necesidades competenciales y el destino de las mismas dentro del ente e i te be

expreso del pnv y de euskal herria bildu y con el rechazo de los trabajadores se ha generado una conflictividad en la radio pública que además de afectar a la prestación del servicio

no prejuzgamos el final del proceso solo sabemos que en ocasiones anteriores

e i te be han acudido a los juzgados estos les han dado la razón y a la empresa le ha supuesto un coste adicional

no incluido en los presupuestos del ente y nos ha dicho que no en vísperas de que se realicen los exámenes y teniendo en cuenta el rechazo sindical y de los trabajadores sabiendo que setenta y nueve trabajadores deben ser despedidos para que las plazas que ocupan sean parcialmente reasignadas

su valoración en relación al coste por las posibles reclamaciones judiciales eskerrik asko unzalu jauna

eman behar en consecuencia el alcance del coste de las eventuales reclamaciones derivadas de la convocatoria de empleo

y de la identificación de las plazas a cubrir o a amortizar en relación a este colectivo aspectos ambos imposibles de determinar a día de hoy

expresamente y explícitamente cuánto va a ser pero creo que es obligación de una dirección responsable hacer una presupuestación de lo que puede venir

con una gestión razonable y rigurosa lo haría estaría pensando en posibles costes derivados de una decisión política que han tomado porque mire usted los socialistas somos conscientes de la necesidad de contar con medios de comunicación públicos y por ello apoyamos que estén subvencionados

que tiene que ser una gestión eficiente la que tiene que hacerse en las empresas públicas el ejercicio pasado una gestión ineficiente del presupuesto de e i te be

incrementando la aportación de cada vasco y vasca a más de cincuenta euros que este año se subvencione con algo más del uno por ciento del presupuesto de la comunidad autónoma vasca

una aportación por cada ciudadano y ciudadana vasca de cuarenta y nueve coma cincuenta céntimos de euro cuarenta y nueve euros y cincuenta céntimos pensamos que exige una gestión absolutamente rigurosa del presupuesto

consejera es notorio nuestra oposición a esta convocatoria pero también

en este caso se nos incrementan las prevenciones con lo que consideramos que está siendo una mala gestión también desde el punto de vista empresarial

qué consecuencias puede tener ni siquiera las indemnizaciones

eliminación de estos contratos nos parece que no ha lugar que no es de rigor empresarial que no es de rigor de gestión y esta mañana se ha hablado con profusión

en cuanto a la gestión de los fondos públicos y para nosotros esto es un ejemplo más un ejemplo más de la falta de rigor y la falta de transparencia en

un mismo escenario desde prismas diferentes lo que e i te be está haciendo no es más que regularizar la situación creada en dos mil diez de laboralización de personal mercantil situación que por cierto no solo ha ocurrido en e i te be si no también en otros medios de comunicación y productoras

a que en el sector de medios de comunicación ha tenido una fuerte presencia profesional el grupo de profesionales independientes egia esan enplegu lehiaketa publiko honen bidez erregularizatu egingo da egoera

empresarial no coincido con usted en absoluto si no todo lo contrario y más en relación al rigor y la transparencia eskerrik asko

eta hau garrantzitsua da se concluye que el área de los montes de álava es una de las zonas de mayor singularidad e interés ambiental de álava y presenta un gran potencial natural con buen estado de conservación cumpliendo así con varios de los criterios orientativos recogidos en el artículo diez de la ley dieciséis barra noventa y cuatro de conservación de la naturaleza del país vasco

y demás recursos geológicos en cualquiera de sus secciones

de dichos yacimientos y recursos baliabide edo tresna erabilgarria da oso eraginkorra

identificables por la belleza de sus paisajes la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora

y que requieren a fin de hacer compatible el aprovechamiento ordenado de sus recursos naturales

estéticos o educativos de una actuación preferente de los poderes públicos hor dago

por todo ello hemos valorado que estando la comunidad autónoma obligada por la directiva hábitat a declarar el entorno como espacio natural protegido

toda vez que la conservación de los valores naturales identificados en este territorio se consiguen a través de su designación resulta oportuno y efectivo para la conservación de los valores insistir en su protección a través de la red natura dos mil y de los instrumentos de los que ya se disponen tanto de los destinados a la conservación de la biodiversidad y sus elementos planes de gestión de especies como también otros instrumentos sectoriales en el área del urbanismo montes agricultura

proponer el desistimiento en la declaración de una figura superpuesta adicional de otra figura recogida en la misma ley con la misma categoría

la de parque natural creemos necesario continuar trabajando con las administraciones afectadas como venimos haciendo todas las administraciones afectadas no el ayuntamiento de vitoria gasteiz en exclusiva poblaciones locales y titulares personales de los terrenos también con el fin de avanzar a mayores niveles de consenso

la figura y los límites concretos del área de protección con ello indicar que hasta este momento se ha dado cumplido trámite a lo previsto en la normativa vasca sobre conservación de la naturaleza

de dieciocho de julio y así pretendemos continuar así pretendemos seguir continuando con el proceso de consultas a todas las administraciones

y a todos los que han presentado alegaciones y sometiendo nuestro informe a tramite de audiencia e informe

en los próximos días próximas fechas eskerrik asko eskerrik asko

bai creo que no es por desconocimiento y espero que sea así el intento que ha hecho usted de mezclar diferentes figuras de protección de la naturaleza el hecho de que estén en el mismo articulo

protegido un árbol singular que son las cuatro categorías de protección

nada tiene que ver con el hecho de que no puedan ser tanto parque natural como un espacio de la red natura dos mil no se superponen ni son contradictorias sino que hacemos con urdaibai por ejemplo que tiene hasta cuatro figuras de protección con txingudi con el parque natural de urkiola o con gorbeia qué hacemos

natura dos mil y quitamos el resto de protección hágalo público y dígalo que es así es mentira pero es que además

lo ocultan que no es la misma protección estar dentro de la red natura dos mil un espacio una red que se creo para crear una red coherente

y ser un parque natural como le he dicho anteriormente el parque natural además toma en cuenta el paisaje los ecosistemas las formaciones geoformologicas etcétera etcétera y sobre todo tiene

que tiene que hacer tiene que intentar compatibilizar el desarrollo económico de ese lugar y la protección de la naturaleza y además tiene otra figura que tampoco existe en la red natura dos mil como son los patronatos que son un fracaso

y eso es cierto pero que si fueran verdaderos lugares de participación para los agentes económicos de su lugar tanto a la hora de crear esos espacios naturales como a la hora de desarrollarlos

en serio dando dinero dando recursos materiales y recursos personales para desarrollar esos parques naturales nada tendría que ver la posibilidad de protección y la posibilidad de compatibilizar el desarrollo económico de un lugar como un parque natural

por lo tanto no sé por qué ustedes interesadamente están intentando enfrentar la figura del parque natural con la de la red natura dos mil en este caso un lic que puede ser una zona de especial conservación sabe qué es

que lo que parece que hay detrás es que ustedes reconocen el fracaso que ha existido en este país en esta comunidad en el desarrollo de los lugares de protección de la naturaleza

de hacer casar el desarrollo económico y la puesta en valor de la naturaleza de esos

tenga su verdadero significado hacer o conjugar el desarrollo económico el social y el medioambiental lo que pasa es que ustedes y en esta comunidad se ha prostituido tanto ese término

como que es sostenible al tren de alta velocidad se dice que también

hasta hace tres días que era sostenible el puerto exterior de pasajes se dice que hasta el fracking es una actividad sostenible porque va a crear

ese término de desarrollo sostenible son incapaces de hacerlo

ahora bien lo que no se puede hacer es mentir titulares como este que aparece hoy

por ustedes o no viendo cuál es la dinámica que ha cogido su gobierno últimamente de la voz de los pueblos de montes de vitoria se hace oír los treinta y seis concejos rechazaron la declaración de parque natural

esto es mentira léanse las alegaciones y no dicen que estén en contra del parque natural una vez más no dicen eso dicen que están en contra de que se haya echo un plan de ordenación de los recursos naturales sin contar con ellos dicen que no quieren que sea una jaula verde donde no puedan desarrollarse económicamente eso es lo que dicen y no dicen que estén en contra del parque natural ahora bien si en álava alguna institución quiere hacer casos a los pueblos no solo a los pueblos de los montes de álava que haga caso a la reivindicación más unitaria

fracking ez esa no tiene ninguna duda esa es unitaria y la han dicho todos los pueblos de álava a ver si su gobierno

los titulares de los periódicos cuando no le dicen lo que usted gusta

porque dicen muchas cosas y a veces cometen imprecisiones

no le gusta estamos trabajando con seriedad en el tema de la protección

estamos trabajando con absoluta seriedad y además teniendo en cuenta precisamente todo lo que usted está intentando poner encima de la mesa de una manera absolutamente tendenciosa estamos trabajando con los siete ayuntamientos afectados ayuntamiento

iruña ocako udala eta iruraiz gaunako udala eta baita vitoria gasteizko udala ere así como las asociaciones de concejos tanto de vitoria como de álava

para analizar conjuntamente el informe de alegaciones que hemos elaborado vistas todas las alegaciones que hemos tenido

referentes al plan de ordenación de los recursos naturales al porn como usted bien sabe vuelvo a traer aquí

en marcha no se ha dejado unilateralmente archivado o en el congelador o como quiera llamarlo el procedimiento sigue en marcha estamos en esa fase de resolución de alegaciones vamos a dar audiencia

para hacer el análisis de todo eso pero además es que lo que estamos haciendo insisto

esta cámara y esta cámara aprobó

una modificación de la ley de mil novecientos noventa y cuatro porque la ley de mil novecientos noventa y cuatro es una ley que es una ley pionera en la protección de la naturaleza es una ley que junto con otras

nuestro territorio vasco sea un referente en materia y en política medioambiental porque lo es le guste o no este territorio es

nuestros espacios la convivencia de nuestros usos humanos urbanos industriales con nuestros valores naturales es modélica y eso es

ocurre y aparece perfectamente definido sean estos rankings propios o extraños nos midamos

otros y decía que no hacemos más que seguir lo que nos pedía esta cámara porque en el debate

el debate que ustedes tuvieron el diez de octubre y al que tuve el honor de asistir y que me gustó mucho es que todos ustedes

de todos los colores nos decían que hiciéramos lo que estábamos haciendo

que no participó porque estaba muy enfadado porque esto no impedía la modificación que se planteaba no iba a impedir taxativamente

nunca en todo el debate se habla de la distinción espacios naturales la misma categoría de protección

que también ya me explicará usted un día si todos los espacios agrícolas son espacios no transformados que de eso también podríamos hablar pero es que todos la señora lópez de ocariz de una manera

nos recordaba y se felicitaba de que se habían modificado aspectos esenciales para clarificar la gestión de las zonas donde se solapan diferentes figuras de espacios protegidos

que lo hiciéramos proponiendo normas reguladoras y mecanismos de gestión coordinados y unificados en un solo documento la señora natalia rojo también nos traía a colación que este era un tema muy debatido en múltiples ocasiones y en opinión del grupo socialistas vascos muy utilizado para confundir a la ciudadanía

totalmente utilizado para confundir a la ciudadanía pero la ley es muy clara y nosotros estamos siguiendo hitzez hitz estamos siguiendo los mandatos de este parlamento y no podemos obviar

afortunada oportuna y que agradezco a esta cámara además eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda